muchas gracias señora presidenta le prometo que no voy a estar veinte minutos nuestras propuestas

evidentemente van en coherencia con el planteamiento que hemos realizado esta mañana y

con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista el otoño pasado y que ahora se está tramitando en las juntas generales de los tres territorios

especialmente en diciembre y en enero sobre el concierto económico queremos volver a poner en valor

y vigente que regula las relaciones financieras y tributarias de los territorios históricos con el resto de españa y por eso nos ha parecido importante

matizar otra vez y que este parlamento vuelva a mostrar su respaldo al concierto económico y el resto de nuestras propuestas como no podía ser de otra forma van tendentes a lo que hemos

se ha exigido un esfuerzo fiscal muy importante a las familias vascas y nosotros entendemos que empieza a ser el momento de devolver ese esfuerzo fiscal y por eso nosotros planteamos ya que hay que empezar a pensar en rebajar el impuesto del irpf especialmente a las rentas

y también nos parece importante porque uno de los problemas que tiene este país evidentemente es el de la población la demografía la pirámide

y entendemos que las ayudas a las familias con hijos las ayudas a la conciliación

que esas ayudas tienen que tener un reflejo mucho mayor en el impuesto de la renta de las personas físicas y a lo mejor menor en las ayudas directas del gobierno vasco

quienes los tienen quienes tienen problemas para conciliar son esas personas y no evidentemente quien no cotiza o quien no trabaja o que lo haga en negro si es que lo hace en negro pero entendemos que no es ahí donde

tienen esos problemas y si queremos fomentar y mejorar tanto los niños y niñas que tenemos que son pocos como mejorar y fomentar la calidad de la dependencia que prestan las familias es evidente que eso tiene que tener un reflejo

del que lo tiene en estos momentos y luego también queremos plantear y hemos planteado la reflexión sobre las rentas del ahorro si es importante para un país tener ahorro porque eso implica que no necesitas pedir dinero prestado fuera

y es evidente que solo hay una medida que lo fomente que son las medidas fiscales y si tenemos una fiscalidad sobre el ahorro peor que en otros sitios

cuando se está planteando que los fondos de pensiones las epsv puedan invertir en empresas vascas

ese recorte que hicimos hace cuatro años hay que volver a quitarlo

que las rentas del ahorro existan

pues a lo mejor lo que hay que fomentar es no gravarlas por segunda vez tan alto comparativamente hablando con los territorios que nos rodean

y en europa no existe y en madrid tampoco

poco sentido tiene fomentar medidas en el irpf para que grandes directivos vengan y les pongamos una exención en el irpf para ver si cogen y viene y se quedan si luego nos asustamos con otras medidas

y que coticen en el país vasco y que no nos ocurra como ha ocurrido en gipuzkoa

ya no están ya no están y también queremos y planteamos que en el impuesto de sucesiones y donaciones entre ascendientes y descendientes tradicionalmente en este país

en madrid y aquí no está exento antes teníamos esa exención para atraer patrimonios que luego

y resulta que ahora nosotros no lo tenemos y el gobierno sabe porque nosotros sabemos

y al partido que sustenta el gobierno y al otro partido que también sustenta el gobierno y si queremos de verdad recaudar más pues habrá que ser atractivos para que venga más gente a pagar que es como se recauda más

por último nosotros evidentemente estamos en contra del fraude fiscal y de la elusión y por eso instamos a las instituciones competentes a profundizar en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal sabiendo que

para intentar que la elusión fiscal y las trampas que hacen algunas multinacionales desviando bases imponibles a otros países donde pagan menos cuando

estas son las propuestas que hacemos en coherencia con lo que hemos planteado esta mañana y

digamos que las propuestas que hemos llegado a un acuerdo y algunas transacciones con los grupos socialista y nacionalista vasco que supongo que las tienen todos ustedes por ahí en otras no pero vamos a apoyar las propuestas de los grupos nacionalista y socialista

son los acuerdos que tenemos básicamente con ellos en materia fiscal y por lo tanto nosotros también cumplimos señora gorospe los acuerdos que firmamos

propuestas de bildu y elkarrekin podemos no solo van en dirección contraria de lo que nosotros proponemos porque ustedes proponen subir todos los impuestos más pero sí tengo que reconocerles

imaginación fiscal y lo voy a dejar así pero bueno las imaginaciones fiscales por muy imaginativo que se crean algunos a la hora de inventarse determinadas figuras tributarias o hacer un planteamiento tan curioso como que el impuesto de sociedades sea progresivo

el catorce o quince y si gana diez millónes paga el treinta es no entender nada

no se miden en función del beneficio final porque a lo mejor si el bbv ganara treinta millónes estaba quebrado porque claro la inversión de capital

el treinta y cinco por ciento ya digo que en fin hay imaginaciones y hay figuras imaginativas que plantean

que es un brindis a la galería pero tienen poca coherencia eskerrik asko damborenea jauna

gure herrialdearen premiei erantzuteko la fiscalidad es una herramienta de primer orden

un modelo de bienestar social para todas las personas es prioritario por tanto contar con recursos suficientes para asegurar los derechos básicos de toda la ciudadanía y actuar en defensa de nuestro tejido productivo por ello será preciso destinar los recursos económicos necesarios al sector público para construir una sociedad más justa

para desarrollar políticas sociales para fortalecer el gasto público y para realizar inversiones socialmente rentables esos recursos deben ser recursos estructurales a fin de asegurar que la supervivencia del sector público se construirá sobre bases sólidas helburuak hauek izanik

arratsaldeko eztabaidari como no podía ser de otra manera

serán debatidas si se le puede llamar de alguna manera hemos tratado de concretar de la mejor manera posible los argumentos que hemos planteado que planteamos ya el viernes y que hemos planteamos también

así hemos registrado cincuenta y cinco resoluciones con el objetivo común de promover un sistema tributario que persiga los fines de suficiencia de ingresos

de redistribución de la riqueza que incentive la actividad económica y la creación de empleo de calidad y que apoye la transición energética y fomente la igualdad

y mujeres cincuenta y cinco resoluciones que pueden dividirse en cuatro

en el primer bloque marcamos trece resoluciones sobre los principios generales que a nuestro parecer debe cumplir cualquier reforma fiscal que sea justa

equidad eficiencia y redistribución de la riqueza pedimos que se promueva una reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto además esta reforma décimos deberá realizarse con el objetivo de incrementar recaudación ampliando la base del sistema fiscal y simplificando el sistema de beneficios fiscales evitando así

de forma que la mayor parte de la carga fiscal no recaiga como ahora sobre los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena y aumente la aportación de las rentas del capital

en presión fiscal con la media de la unión europea instamos también a que se realice una evaluación con perspectiva de género de las políticas fiscales que se aplican en la comunidad autónoma de euskadi analizando como decíamos a la mañana los diferentes impactos que en función del género tiene las cargas y los beneficios fiscales solicitamos la elaboración en un plazo de cuatro meses de una guía que incorpore metodología y recomendaciones de políticas fiscales con principios y métodos feministas

plazo de cuatro meses un análisis de impacto sobre el cambio climático que tienen las normas fiscales que se aplican en los tres territorios históricos

el efecto de los tributos indirectos y de las exenciones deducciones y bonificaciones fiscales aplicadas a las personas físicas y jurídicas

comportamientos perjudiciales para el medio ambiente que contribuyan al cambio climático o que supongan el uso desmedido de recursos naturales no renovables

social de género y medio ambiental en todas las partidas de gasto superior a cinco millónes de euros que deben ser aprobadas por el consejo de gobierno en un segundo bloque enmarcamos una resolución en relación a la armonización colaboración y coordinación fiscal la resolución

desde el órgano de coordinación tributaria el desarrollo de la ley tres barra mil novecientos ochenta y nueve de treinta de mayo de armonización colaboración y coordinación fiscal

los trabajos técnicos precisos puedan elaborarse las disposiciones normativas correspondientes para coordinar y armonizar la política fiscal en euskadi en base a tres orientaciones muy claras

en el plazo de tres meses trasladándose al parlamento vasco a los efectos oportunos elaborar también en el plazo de seis meses

que sean precisas para desarrollar la ley tres barra mil novecientos ochenta y nueve de armonización colaboración y coordinación fiscal trasladándolo también al parlamento tercer bloque

y limitar la elusión fiscal planteamos fijar objetivos

erradicación del fraude fiscal fijando como un primer objetivo recuperar el sesenta por ciento del fraude total en los impuestos generales gestionados por las administraciones vascas en el informe sobre economía sumergida y fraude fiscal en euskadi también planteamos dirigir la inspección fiscal hacía la investigación de quienes más defraudan grandes empresas grandes patrimonios testaferros

sociedades que a su vez tienen filiales en paraísos fiscales o territorios de tributación agresiva proponemos que se publiquen las listas de personas y empresas morosas

euros proponemos ampliar la participación en la comisión de lucha contra el fraude fiscal

a los agentes políticos sindicales y socioeconómicos en las reuniones de dicha comisión con capacidad de presentar propuestas de acciones a realizar para el objetivo de erradicar el fraude fiscal que tengan carácter vinculante dentro de los acuerdos de la comisión creemos imprescindible crear el observatorio de luchas

compuesto por personas expertas independientes para la realización de estudios e informes específicos con el objetivo de analizar

y medir el fraude fiscal en los diferentes territorios históricos así

erradicación del mismo nos parece imprescindible la investigación del fraude fiscal derivado del fraude laboral relacionado con el menor pago de impuestos en relación a trabajo sumergido contratación temporal y a tiempo parcial fraudulenta exceso de horas extraordinarias y no declaradas

irregularidades que podemos contar con transcendencia fiscal para luchar contra

un plazo de tres meses desde la comisión de lucha contra el fraude fiscal una lista de personas físicas empresas y sociedades

de euskadi y a su vez tienen filiales presencia o intereses en paraísos fiscales creemos además

debe disponer de agentes dedicados y formados exclusivamente

duplicando la dotación presupuestaria específica y de personal adscrito en los siguientes bloques planteamos resoluciones para impuestos concretos apostamos por la progresiva convergencia en la tributación del impuesto sobre la renta de la personas físicas

rendimientos de capital y rendimientos de las actividades económicas y las rentas del trabajo en el irpf que proponemos nosotros proponemos que se eleve el mínimo exento en el impuesto a los catorce mil euros para las rentas del trabajo que una persona que gane mil euros al mes no tenga que pagar impuesto sobre

por otro lado proponemos que haya modificación normativa de los tramos de las rentas más altas de forma que incrementen su contribución también proponemos eliminar la exención por dividendos y participaciones en beneficios

en el impuesto de sociedades planteamos la progresiva convergencia de la presión fiscal señor damborenea yo no hablo de recaudación normalmente bueno también pero esta vez de presión fiscal yo a usted y a la señora castelo les apuesto una cena que la presión fiscal en el impuesto de sociedades

pensamos que el impuesto de sociedades debe converger progresivamente en presión fiscal con la media de la unión europea pensamos que es fundamental también aplicar el tipo más alto que se da en el impuesto sobre la renta de la personas físicas

sin actividad empresarial sociedades ficticias interpuestas o instrumentales sin fines productivos y también a las que se dediquen únicamente a la gestión de patrimonios personales creemos que es necesario subir el tipo general

asumiendo además el objetivo de incrementar paulatinamente un tipo impositivo hasta el treinta y cinco por ciento para converger en presión fiscal con la media de la unión

y hemos presentado muchas proposiciones muchas resoluciones que han sido aprobadas previamente en otros plenos monográficos por lo tanto yo hoy no entendería que no

pero parece que hoy el gobierno se retrata el rodillo del partido nacionalista vasco y del partido socialista con el apoyo del partido popular lo tumba todo aquí da igual sea lo que sea que lo tumba todo da igual que sea su propio programa electoral que también lo tumba

su vieja política la de sus intereses partidistas en vez del interés general o de los principios porque me parece impresionante

en elkarrekin podemos por lo menos nos tomamos en serio nuestro trabajo y votamos en consecuencia con nuestros principios

pero ustedes ni nos han llamado señora castelo le he dicho dos veces a ver cuándo nos reuníamos ni nos han llamado no lo entiendo

porque hace falta política con principios política fiscal con principios algunos

ante la ciudadanía diciendo una cosa y luego a las instituciones haciendo la contraria y esa es su palabra una palabra que no vale absolutamente nada

no vale defender lo indefendible no vale luego en el pasillo que que mal nos va que esto no es lo que quería eso no vale señora castelo

y tumban todas las aportaciones del resto de los grupos progresistas da igual si son las que se comprometieron ustedes en el programa electoral o no que ustedes las tumban igual igual y luego pretenderán defender eso ante la ciudadanía verdad

y esa es su forma de hacer política no la nuestra desde luego votaremos en consecuencia con nuestros principios y nuestras ideas

dignificando el valor de la palabra comprometida con la ciudadanía dignificando la defensa de los intereses de la ciudadanía que no solo confió en nosotras sino que votó progresismo en este país y que hoy se siente huérfana

una vez más otra vez más con la derecha más rancia y no se puede llamar uno socialista

y señores del partido nacionalista vasco esa es su auzo lan y su gobernanza el rodillo parlamentario junto al partido popular

voy a bajar el tono porque hemos empezado todos con un tono bajo y hemos acabado

le está afectando bueno yo habiendo hecho repaso de la hemeroteca lo que había comprobado es que este segundo turno normalmente las formaciones políticas a lo que se dedicaban porque ya habíamos tenido

nuestras diferencias y nuestras posibilidades de encuentro a explicar las propuestas de resolución que se había presentado y lo voy a hacer pero hombre no antes sin decirle alguna de las cuestiones que usted ha mencionado de forma

yo ya sé que usted esta mañana me ha cerrado aquí la intervención señor bollain diciendo que animaba a los socialistas a mantener relaciones abiertas

y aunque nosotros pudiéramos aceptar su invitación ha de comprender y yo imagino que lo comprenderá

solamente es poco tiempo para adaptarse a una relación abierta claro que sí que es verdad que sí es cierto que su interés hubiese sido sincero si hubiese sido leal si hubiese sido con intención de llegar a un acuerdo con esa figura de mano tendida que me ha dicho usted durante toda la mañana seguramente no hubiera rechazado un pleno monográfico de fiscalidad hace un año a propuesta del partido nacionalista y del partido socialista

realmente sus propuestas pues seguramente en vez de habérselas entregado a la prensa el viernes y a nosotros hoy hace escasamente dos horas

y hubiesemos podido trabajar el resto del tiempo pero no era eso lo que usted está y aún a pesar que de esa lectura rápida que he podido realizar yo en este tiempo de sus propuestas y de algunas de eh bildu pudiéramos tener

cuestiones filosóficas que hemos compartido como hemos compartido también aquí esta mañana hay otras cuestiones de redacción que usted dice que no equivoca pero equivoca y cuando usted habla de tipo de presión o de base a veces no habla de lo que quiere

ustedes esta izquierda pura y casta recién llegada realmente quiere llegar a un acuerdo con fuerzas progresistas de este parlamento pues con esto que han traído hoy como documento de base empiecen a trabajar porque van a tener ustedes una nueva oportunidad de

en qué se destinan los recursos de las administraciones públicas en el presupuesto del diecinueve y si usted ha visto también las propuestas del partido socialista

que cerramos también con un nuevo horizonte de evaluación pero ya le decía también esta mañana que nosotros confiamos y creemos

de las políticas que ponemos en marcha también las políticas fiscales dentro de un escenario lógicamente de estabilidad necesaria de la normativa tributaria

en su momento mencionar por tanto de trileros institucionales si tendríamos que hablar estaríamos hablando de elkarrekin podemos

como propuestas de resolución y explicadas por usted a lo realizado por ustedes en como cuando gobiernan en navarra hay un trecho muy muy muy y me quedo corta en el que seguramente durante todo ese recorrido igual nos podríamos encontrar

verdad como diría mi hija pues como de la noche al día en fin yo a lo que venía hoy aquí en este segundo turno y con un debate tranquilo

bastante menos propuestas que las suyas porque consideramos primero que las propuestas que se aprobaron en el pleno monográfico del año dos mil trece que dieron lugar a la reforma del dos mil trece están plenamente vigentes y que solamente introducíamos aquellas fueran necesario o ratificábamos algún principio básico porque nos ha dado la sensación que durante los debates de este último año algunas formaciones políticas no les ha quedado claro

la política fiscal y por tanto nosotros en estas resoluciones que hemos presentado

de principios y declaraciones generales para determinar con claridad

para lograr mayor igualdad solidaridad y justicia social y por tanto para construir una sociedad más justa en la que ningún ciudadano o ciudadana quede abandonado

para dotar de recursos suficientes que sustentan el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas y porque ello nos ayuda a redistribuir eficazmente la riqueza entre la población y para que con ello también podamos impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo me imagino que dentro de esa valoración de votaciones que ustedes han realizado

encontrar por tanto ningún miedo a que si coincidimos aquí y no salen otras cuestiones queda recogida la filosofía principal que es lo que supuestamente debemos de pedir

todos más o menos claras por otro lado

que en base a esos compromisos que hemos adquirido consideramos que la reforma de la normativa tributaria realizada en dos mil trece

y de los servicios públicos esta mañana desde luego me he extendido

en ese argumento hay un segundo bloque que hemos destinado al fraude fiscal porque tal y como les comentaba esta mañana para nosotros esa ha sido es y será una prioridad

y seguramente ahí tengamos tiempo para trabajar entre las propuestas presentadas por eh bildu las presentadas por elkarrekin podemos y las presentadas por el grupo

popular con lo cual tampoco hoy acaba el mundo aquí por ello

que en el dos mil trece ya se inició este camino que hoy damos unos pasos y que a mí sí que me gustaría destacar una de las medidas que nosotros presentamos con respecto al tema del fraude fiscal y porque les he visto que ustedes insisten no les voy a dar los argumentos porque para eso podemos tirar del archivo

por qué no el por qué sí ustedes el por qué no nosotros lógicamente de la necesidad de un observatorio de lucha contra el fraude fiscal y es porque ese observatorio

con la comisión de lucha interinstitucional contra el fraude fiscal y por ello una de las propuestas lo que viene a incorporar

que no tenía esa comisión interinstitucional que era la capacidad de encargar informes sobre lo que es la economía sumergida y el fraude fiscal

de juicio a la hora de poder seguir impulsando medidas en la lucha contra el fraude fiscal continuamos también o creemos importante

sea una de las medidas apoyadas en que es necesario seguir impulsando la implantación de la educación tributaria en la enseñanza fundamentalmente porque

lo que haga es ayudar a combatir esa conciencia colectiva que en este momento existe

con el fraude siempre un conocimiento ayudará a un cambio también de conciencia

importantes pero a nosotros sí porque nos preocupa el fraude grande

el sistema y daña a los servicios públicos y a las prestaciones que hemos de dar para

por tanto continuamos también con el tema de los convenios de intercambio de información el refuerzo de la cooperación administrativa y la asistencia mutua los intercambios automáticos y un control de las transacciones en efectivo que consideramos es una

el fraude hay un tercer bloque que recoge las bases de la actualización normativa tributaria que hemos acordado tras el análisis que hemos hecho de los datos del año dos mil trece y que van encaminadas fundamentalmente al impuesto de sociedades verdad y estas bases o criterios generales

no menoscabando la recaudación fiscal y permitiendo la financiación de los servicios y políticas públicas también

necesario es que se avance en el principio de que las empresas que obtengan beneficios

sí o sí una tributación efectiva determinada por lo que todas las deducciones y todas las compensaciones deberán estar constreñidas por ese límite

que debe de trasladar a las rentas medias y bajas una merma de sus ingresos y debe favorecer el ahorro y la inversión y también debe facilitar y mejorar o no perjudicar la competitividad de las empresas también debemos de seguir introduciendo medidas para evitar la elusión fiscal la evasión fiscal

artificioso de los beneficios empresariales alineándonos

fiscales europeos esos a los que ustedes tanto nombran y por tanto lo que hacemos es comprometernos como ya le he dicho también como ya les he dicho también a una nueva evaluación en el horizonte

bajaba yo también con ánimo señor bollain de aceptarle la apuesta porque a mí no me da miedo aceptar las apuestas que me dicen pero como luego ha considerado que somos todos unos trileros institucionales tampoco

mejor hace usted un tema de mejorar en su capacidad de acuerdo y en su voluntad a la hora de relacionarse con el resto de grupos y seguramente seguramente consiga mejores objetivos de lo que hasta ahora su formación política

handitzea zabaltzea uno de los éxitos del anterior debate en relación con el sistema tributario fue la constitución de la comisión de lucha contra el fraude fiscal en el seno del órgano de

y en las propuestas de resolución que se presentan hoy pedimos la ampliación de sus funciones para que se pudiera realizar la incorporación de estudios periódicos estudios que a nuestro juicio deberían realizarse con operaciones estadísticas para la medición de la economía no observada siguiendo la recomendación de la ocde

datos que puedan ser interesantes con esas operaciones estadísticas por otra parte hemos metido

propuestas varias propuestas con carácter general pero alineadas con esa reforma con esa actualización que se está en este momento debatiendo en

decía antes que vamos a respetar el ámbito competencial y también el acuerdo que hemos adoptado y nos vamos a respetar y nos vamos a

a los términos en los que ese acuerdo se ha cerrado por tanto apoyaremos aquellas propuestas de resolución que hemos presentado conjuntamente el partido socialista y nosotros el partido nacionalista vasco

que hemos firmado con el partido popular votaremos en contra del resto de propuestas de resolución y me gustaría pararme en particular

en la propuestas presentadas por el partido popular con ustedes

resolución que con el horizonte del dos mil veinte nos comprometíamos a hacer una evaluación de todo el sistema fiscal conjunto integral una evaluación que tal vez nos pudiera llevar también a una

que abordara a distintos tributos a distintas figuras impositivas entre ellas el impuesto de la renta de las personas físicas ustedes en las propuestas de resolución que nos presentan van un poco más allá de lo que hemos acordado nos están

que adoptemos y que apoyemos medidas concretas en relación con algunos impuestos fuera de lo que hemos acordado y es un sinsentido no tiene ningún sentido que digamos que en el horizonte de dos mil veinte vamos a analizar y evaluar en profundidad todo el sistema tributario para a

impuestos determinados aspectos de unos impuestos bajen o suban es una contradicción no tiene sentido es decir o esperamos y evaluamos y tomamos decisiones o tomamos decisiones independientemente de lo que se pueda evaluar no tiene ningún sentido por tanto votaremos

y sí me gustaría decir que en particular y en la enmienda de que hemos firmado con ustedes agradecemos a la sociedad vasca en general y en particular a las familias vascas el esfuerzo que durante los años de la crisis económica

en muchos casos para poder entre todas y todos salir hacia adelante que pronto el veintiuno de marzo tendremos en esta cámara

un pacto que es determinante para el gobierno vasco donde se abordará y se hará un análisis y también en otros ámbitos de la comisión y en el pleno pero un análisis de lo que debe ser políticas públicas para favorecer a las familias porque medidas aisladas única y exclusivamente abordando el ingreso no tiene sentido si es un pacto interinstitucional si es un pacto

nos que exige que hagamos un enfoque global y que tomemos decisiones conjuntas tal vez de ingresos tal vez sí tal vez de gastos

y tomemos decisiones globales integrales para acertar en esas políticas de familias que lanzaremos no

con el único objetivo de tener un titular eskerrik asko eskerrik asko gorospe

muchas gracias señora presidenta señor bollain dice que lo tumbamos todo y no sé si es la palabra adecuada

este debate ahora bien en materia de fraude fiscal y las propuestas que ustedes hacen es difícil en algún caso tomárselo en serio

estudiar nosotros en materia de fraude fiscal lo que hemos planteado siempre es que hay que actuar y cuando nos dicen que tiene que ser por personas expertas e independientes

porque claro a los que se les pilla pues o no son tan expertos o no son tan independientes y cuando hablaba de

que cuando usted nos pide que nos gastemos dinero en una campaña institucional en los paraísos fiscales para que aquellas personas o empresas que están domiciliadas allí

o sea no solo no pagan impuestos sino que encima nos proponen que nos gastemos el dinero que los contribuyentes pagamos aquí en estas cosas es complicado es complicado que no se lo rechacemos y el resto de sus propuestas con perdón intentan revisar el acuerdo fiscal que se está tramitando en las juntas generales en estos momentos sí todo lo que tienen del impuesto de sociedades es lo contrario hasta proponen el treinta y cinco por ciento en el tipo qué quiere que le diga

pero también le diré que nosotros en fin la evaluación de la recaudación de la reforma del

y yo le he explicado esta mañana qué ha ocurrido

cada ocupado en el país vasco cuánto paga más de irpf

yo he explicado cómo hemos perdido contribuyentes altos en gipuzkoa en un año seiscientos cuarenta pero los hemos perdido también en álava y en bizkaia y se han ido a madrid

y ustedes también ya sé el compromiso que hemos tenido que hasta dentro de dos años

si se puede hacer antes se haga antes y además le décimos en qué dirección le décimos en qué dirección

porque lo venimos planteando de siempre porque nosotros hicimos esa evaluación también a la par que las diputaciones después que las diputaciones en el mes de julio

pero después de ver los informes de las diputaciones es decir sí sabemos y sí lo tenemos evaluado y sabemos lo que ha pasado y qué ha pasado con el irpf y qué ha pasado con los demás impuestos

y con el de patrimonio y nosotros queremos que aquí y lo he dicho esta mañana ojalá tuviéramos muchos ricos

en vez de espantarlos como los espantan estos que luego tenemos que pagar los demás más ese es nuestro planteamiento claro

que amancio ortega estuviera aquí domiciliado por ejemplo en bilbao

botín verdad por qué porque recaudaríamos más y a lo mejor conseguiríamos pagar menos todos los demás

es espantar a esos pues mal vamos porque si los que más pueden pagar dejan de pagar aquí y pagan en otro sitio

que los que estamos aquí y pagamos aquí tenemos que pagar más para mantener todo ese gasto social en el que supuestamente estamos todos de acuerdo en mantenerlo

y poco más tengo que decir nosotros sí que nos gustaría señora gorospe que la fiscalidad que tenemos

y además cuanto antes cuanto antes y estoy seguro de que usted también eskerrik asko damborenea

porque si no una de dos o no tenéis ni idea de política fiscal y algo sí que sabéis por lo menos cómo ayudar a los vuestros

si me dices que votar en contra de que el sistema fiscal es un instrumento importante para la consecución de la justicia social el reparto de la riqueza y la reducción de la brecha social existente

bien y si te parece normal votar en contra de que el estado del bienestar social y digno es prioritario para contar con recursos suficientes para asegurar los derechos básicos de toda la ciudadanía

de nuestra red productiva que es algo que siempre nos achaquéis que nos olvidamos pero no nos olvidamos

bien pues debe de ser que esas cosas no son importantes claro es que hay que tener firmado un pacto entonces no venimos a hablar de política fiscal lo único que han venido ustedes es a llevar sobre la mesa

yo sí me las he leído les tengo que decir que algunos principios en el folio quedan bien

pero el problema es que luego ustedes cuando plantean políticas fiscales se le olvidan esos principios se les olvidan

todo lo contrario por lo tanto sobre esos principios asumiendo que son principios generales de la política fiscal pues evidentemente no nos vamos a posicionar en contra porque nosotros sí hemos leído las propuestas

por donde aquel sí vamos a apoyar sí vamos a apoyar una propuesta de resolución suya

la implantación gradual de la educación tributaria en la enseñanza no universitaria

cuando todos ustedes saben también como yo porque lo hemos leído todos

la comisión de lucha contra el fraude explicando cómo estaban aplicando una unidad didáctica en los diferentes centros de educación que se habían adherido a este programa

puesta en vigor por la hacienda de gipuzkoa por cierto cuando gobernaba euskal herria bildu por cierto y es exactamente esa unidad es exactamente esa unidad didáctica

en los diferentes o la que se está enseñando los diferentes centros de educación adheridos a este plan pero bueno está bien está bien estoy segura de que

en otro pleno monográfico y ustedes votaron en contra y ahora está aquí y ustedes la presentan estoy segura de que muchas de nuestras propuestas de resolución dentro de cuatro o cinco o seis años cuando ustedes evolucionen pues también las firmarán berbotsa y lo he dicho

que ustedes luego se desdicen no es que encima en algunas de las propuestas de resoluciones suyas mezclan conceptos económicos

al portavoz de podemos en algún momento y sin ningún rigor yo no voy a decir eso yo no voy a llegar a esos puntos pero la verdad es que están planteadas de una manera poco correcta podría decir no pueden decir que la política fiscal puede hacer o no va a hacer porque ustedes van a hacer todo lo posible para que no lo hagan

mermen sus ingresos no no si los ingresos merman porque ustedes se dedican a aplicar otro tipo de políticas de empleo

son las políticas de empleo las políticas de trabajo las que merman los ingresos de las personas y hay otra por ahí que también tiene tela marinera pero como ya ando escasa de tiempo

que igual para alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando pues en la misma frase pueden parecer lógicos pero no tienen ningún sentido económico y bueno ya la trece ya es de nota

valoren ustedes instituciones quizás si a lo mejor es posible

una actualización de la normativa tributaria pero si se lo ha dicho el señor damborenea que se lo ha puesto encima de la mesa

sí o sí eskerrik asko pinedo

me parece alucinante me parece alucinante están seguras que ustedes han leído las resoluciones que hemos presentado porque

veintiséis son resoluciones que se debatieron en los últimos plenos monográficos y quedaron aprobadas ya está pero no se están llevando a cabo entonces es puro cinismo político vamos yo no entiendo el tumbar por tumbar aunque se esté de acuerdo

estoy seguro que en algunas de estas resoluciones tanto partido nacionalista vasco como el partido socialista están de acuerdo es decir nosotros

resoluciones con las que estemos de acuerdo por poner un ejemplo

tiene usted estos días estos mismos días a su secretario general pedro sánchez de gira por el estado español

aquí aliados con el partido popular van a votar que no créame que de verdad me cuesta mucho me cuesta entenderlo

el único que habrá recibido la llamada de ustedes habrá sido el partido popular de gobierno a la señora castelo se lo he dicho dos veces a ver si nos reuníamos tampoco

ustedes votaron a favor de crear un foro permanente en la cámara para el debate fiscal

no hay foro permanente pero hoy ustedes votan que no por qué

ustedes votaron a favor de realizar informes coste beneficio de partidas

no se realizan no se realizan en la actualidad y ustedes votan que no resolución trece numero trece de las que hemos presentado ustedes

de armonización colaboración y coordinación fiscal podría explicarlo por qué

votaron a favor de la investigación del fraude fiscal derivado del fraude laboral

que no se está haciendo en la actualidad y hoy votan en contra

señora castelo ustedes votaron a favor de la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarios de las haciendas forales el veintiuno

y hoy votan en contra en serio señora castelo ustedes también votaron a favor de revisar todos los regímenes especiales

y manteniendo aquellos que por su carácter social o sectorial aportan un mayor beneficio a la sociedad y hoy votan en contra

realizando en la actualidad ahí está el problema que votan a favor de algo que hoy en día no se realiza pero hoy

votáis en contra qué pasa que en gobierno las cosas se ven de otra manera o quizás esto probablemente además esté más acertado

que tienen unos principios pero que sí no les gustan tienen otros eskerrik asko eskerrik asko

terminando y soy capaz de centrar alguna cuestión brevemente y sin alterarme

señor damborenea yo no sé de dónde saca usted

datos de irpf y ocupados qué tiene que ver los ocupados con los contribuyentes del irpf el irpf es el impuesto de las rentas de las personas físicas y tanto ocupados como no ocupados por tanto usted no me puede hacer esas simetrías aquí y además

y yo le he entendido el juego cada uno ha utilizado los datos que les ha parecido y usted le venía bien ese

pero bueno como les he dicho yo esta mañana no es decir una cosa por mucho que se repite no se hace verdad sobre todo cuando saben que parten de planteamientos falsos

que usted ha comentado también de la evaluación que se hizo por parte de las juntas generales que usted ha podido ver igual que he podido ver yo y es que se produjo un incremento de la recaudación

en esos tramos y se ha ampliado la base de contribuyentes es decir no se nos ha escapado ninguno por aumentar la progresividad en esos tramos del irpf eso datos los he visto yo y los ha visto usted con lo cual

yo creo que sea necesario yo ya sé y se lo he dicho esta mañana no lo voy a repetir ahora tenemos una concepción diferente de lo que es el tema impositivo y eso usted prefiere que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos de los que se puede quedar lógicamente porque no todos tienen lo mismo y nosotros preferimos a la redistribución de la riqueza a través de la prestación de servicios públicos de sanidad sin copago de educación para todos etcétera bueno se lo he explicado esta mañana yo creo

y luego con respecto a la señora pinedo de eh bildu solamente un par de cuestiones

su documento y leo lo que han hecho en navarra a alguien se le han olvidado los principios entonces me imagino que son ustedes los que han perdido los principios

hasta esa parte de los compañeros que tenemos al lado o es que allí les ha condicionado a ustedes el partido popular han llegado ustedes allí a un acuerdo y por tanto aquello se parece mucho

a qué se han condicionado a lo que decía podemos lo que decía eh bildu

tranquilamente el turno de intervención y he tenido que escuchar vamos que casi me desgastan ustedes hoy el apellido

en ninguna materia ni estamos aquí por robar ideas es decir cuando hablamos de la educación tributaria usted estará convencida que esto nació en gipuzkoa y yo estoy convencida que desde que entre en el año

de la comisión de hacienda la educación tributaria pero bueno esto no es una cuestión de medallas es una cuestión de que se haga porque nosotros y seguramente también ustedes están convencido que la educación tributaria

el fraude fiscal entonces nosotros no evolucionamos

firmes yo creo que eso espero que les quede claro igual ustedes no y por eso están en esa evolución constante de lo que hacemos en esta tribuna y de lo que hacemos

con eso y no creo no creo que usted esté en contra de evaluar las políticas públicas que se ponen en marcha

y señor bollain voy a terminar con usted me quedan cincuenta y tres segundos creo que me sobran para decirle lo que le tengo que decir mire

ratificándonos permanentemente en lo que ya tenemos aprobado usted ha copiado qué ha dicho la mitad de las propuestas pues las podía haber ahorrado porque esas ya les tenia aprobadas ya se aprobaron

a aprobar y hay que decir una cosa usted baja aquí a una tribuna de un parlamento no a la tribuna de un mitin entonces el día del internacional del teatro

hombre yo creo que tenía usted tiempo para practicar en casa sin necesidad de haber utilizado esta tribuna

para esos méritos yo aquí lo que le sigo

es que en gobierno las cosas sí que deben de cambiar porque el partido al que usted representa de elkarrekin podemos en navarra que gobierna

no ha aprobado lo que usted aquí nos propone eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

y hemos dicho que venimos a dar babesa cobertura política también desde esta

esta mañana decía primero entre instituciones y después entre partidos políticos con las enormes dificultades que eso tiene y nos faltaba evidentemente esto es una

de que queremos llegar a algo cuando el escenario de negociación

acuerdo ha sido otro ahora si efectivamente como le acaban de decir de lo que se trata es aquí de hacer una teatralización absurda que no lleva a nada pues podíamos haber hecho ese juego y a que nos lleva más que a perder tiempo usted y a perder tiempo nosotros venimos a darle ese apoyo político sin más bilakaera evolución

esateko cuando ustedes evolucionen y ustedes nos hablan de evolución eskerrik asko bakarrik gauza bat esan lehenengo txandan erratu naizela